osasun arazo larriak ekarri ahal ditu la oms considera el alcohol como una de las drogas

así lo subrayaba en su último informe el alcohol es actualmente el tercer factor de riesgo más importante para la salud por detrás del tabaco

su consumo ante los menores de edad puede tener consecuencias inmediatas y graves así como consecuencias perjudiciales

han cambiado especialmente entre la gente más joven el patrón actual se sitúa en lo que ha venido un consumo recreativo asociado al tiempo libre cada vez más temprano

quisiera subrayar también la baja percepción del riesgo existente entre los jóvenes por darles algunos datos de nuestra realidad concreta actualmente

alcanza la mayoría de edad habiendo probado el alcohol un tercio de las personas

confiesan beber algo los fines de semana la edad media de inicio se situó en la encuesta euskadi y drogas del año dos mil doce en catorce coma ocho años

se ha elaborado el programa menores y alcohol presentado ante el consejo de gobierno el pasado veintisiete de mayo en cuadrado en el plan de salud dos mil trece dos mil veinte contemplando el sexto plan de adicciones dos mil once y dando continuidad a las iniciativas que en los últimos años se han desarrollado desde distintos ámbitos para abordar este problema el objetivo principal del programa es atajar el consumo del alcohol entre nuestros menores y también abordar el clima de tolerancia

el programa se ha concebido desde un abordaje de coordinación interinstitucional e intersectorial

a desarrollar en el horizonte de esta legislatura las propuestas están agrupadas en seis ámbitos comunitario educativo sanitario adicciones

y difusión social por destacar alguno de los objetivos serían intensificar la acción institucional ante el consumo de alcohol disminuir el número de menores que lo consumen y retrasar la del inicio del consumo abordar los problemas asociados

incrementar la planificación de la participación de los jóvenes en las políticas de salud mejorar el conocimiento del riesgo del consumo por parte de los menores

que rechace el consumo de alcohol por los menores desde la aprobación del programa se han empezado a implementar medidas concretas para hacer el seguimiento coordinación

integrada por los diferentes departamentos del gobierno diputaciones ayuntamientos y los propios jóvenes a través del consejo de la juventud bukatzeko

etorkinen kolektiboak horrela onartu dute horrela onartu dute berarekin bilera egin ondoren soy muy claro en relación a este tema considero totalmente las palabras del alcalde de sestao ni las palabras ni las formas fueron correctas

la desautorización a estas declaraciones por parte del propio partido nacionalista vasco ahora bien el propio alcalde ha asumido que fueron inadecuadas y ha pedido disculpas y lo ha hecho de inmediato y con sinceridad me parece importante resaltar

han aceptado sus disculpas y han reconocido la trayectoria de josu bergara como persona cercana y comprometida con sus necesidades

los responsables públicos deben ser ejemplo de convivencia evitando expresiones y posicionamientos que creen dolor y frentismo estamos convencidas y convencidos de que en ningún caso el fin justifica los medios estas no son palabras de euskal herria bildu son palabras de cáritas bizkaia

apelan a las instituciones públicas a garantizar el acceso a los derechos básicos como es el derecho al empadronamiento que a su vez da lugar a derechos como

sociales y como ayudas de emergencia social porque son varias las familias que han solicitado en reiteradas ocasiones empadronarse

les ha negado dicho derecho quién y el anterior director de igualdad y de

reunión para abordar el incumplimiento sin ningún tipo de éxito hay escritos en el ayuntamiento de las propias familias y la opción que les quedaba era la denuncia por no hablar del ararteko quien ha intervenido de oficio varias veces en sestao la última vez

la última vez ayer para hacer requerimiento sobre el empadronamiento de estas personas la situación de regeneración del municipio además de cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana este incumplimiento consciente y de modo reiterado de la ley por parte de bergara debería haber traído consecuencias políticas no cree señor urkullu

y económica lastrado por una tasa de paro del veintisiete por ciento resultado de las nefastas políticas que durante décadas se han llevado a cabo convirtiendo a sestao en un desierto industrial

lo que nunca se puede hacer es ligar inmigración con delincuencia de modo generalizado y peor aún caer en planteamientos xenófobos y excluyentes creen que solo con más policía en la zona se solucionará el problema de sestao

incluyentes educación en la convivencia y personas capaces de gestionar los problemas y sobre todo con la implicación de las vecinas y vecinos

la inserción de ciento cincuenta personas considerado como modélico por el ararteko donde también participan ustedes

que da buenos frutos y a la que ningún alcalde de sestao ha querido

usted como máximo responsable tiene que velar por la garantía de todos los derechos para la sociedad vasca y por ello le emplazamos a que hoy aquí se comprometa ante los movimientos sociales el ararteko y las formaciones políticas

estas personas van a tener derecho a lo que por derecho propio les corresponde que es el empadronamiento besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

señora diana urrea el posicionamiento del pleno de sestao también ha sido claro el del pleno de sestao y ustedes han presentado una moción de reprobación contra el alcalde

de los veintiuno corporativos respeto esa decisión institucional y usted debería respetarla también en el contexto que se vive en sestao sestao

habla usted de sestao sestao ha sido siempre un municipio de acogida siempre

no de exclusión un municipio de integración el problema que abordamos señora diana urrea es de delincuencia de incivismo de personas que no respetan

y el gobierno vasco está comprometido en la solución de este problema trabajamos por la integración y la cohesión social señora diana urrea

trabajamos por la reactivación y el empleo ertzaintza y policía municipal están trabajando de la mano nuevas medidas de seguridad y protección de las personas estamos comprometidos con los valores de la equidad y la justicia social desde lo que es la actuación del gobierno vasco

rechazo nuevamente las declaraciones inadecuadas del alcalde como rechazo también señora diana urrea la utilización partidista de unas grabaciones realizadas hace un año que han sido manipuladas y dadas a conocer cuatro días antes de unas elecciones se ha producido un cálculo injustificable por parte de alguien que pretende ahora subrayar

señor lehendakari el pasado catorce de mayo anunció que el gobierno vasco alcanzaría el déficit cero en tres años para dos mil dieciséis es decir coincidiendo

según lo determinado por el gobierno de españa y en cumplimiento de los planes de estabilidad y los socialistas queremos saber

si va a suponer nuevos sacrificios en el gasto público y en las prestaciones de servicios que deben recibir a nuestro entender los ciudadanos vascos o si por el contrario se propone evitar los sacrificios sociales por la vía de aumentar los ingresos a través de una fiscalidad progresiva

con recursos suficientes de acuerdo con el compromiso que su gobierno tiene contraído con nosotros por eso señor lehendakari queremos que usted nos aclare

está pensando en nuevos sacrificios de gasto público que afecte a los servicios públicos esenciales eskerrik asko pastor jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor pastor yo no dije que dentro de tres años alcanzaríamos el déficit cero dije que me parecía razonable que dentro de tres años podamos alcanzar el déficit cero creo que los matices son importantes

ni de fórmulas para cumplir los objetivos de déficit sino fuera una obligación constitucional señor pastor una obligación que propuso su partido ayer hizo usted referencia a ello el partido socialista obrero español y pactó con el partido popular reformaron juntos la constitución con urgencia y sin consulta en agosto de dos mil once cuando quiere se puede señor pastor en todo caso derivado de ese compromiso constitucional

hemos alcanzado un acuerdo en la comisión mixta del concierto y para mí eso también en el cumplimiento del objetivo del déficit fijado para el año pasado y así resuelto es ley tercero seamos honestos y reconozcamos que el año dos mil trece el año pasado el gobierno garantizó los servicios esenciales disponiendo de mil cien millónes menos de presupuesto en ingresos comparativamente con el año dos mil doce señor pastor

hemos controlado el gasto y ahora vamos a mejorar los ingresos este camino está pactado aprobado y en marcha contamos con tres medidas la reforma fiscal la lucha contra el fraude y el programa de empleo y reactivación usted y nosotros hemos aprobado este camino y sabe que da ya sus frutos percibimos un cambio

y esto creo que permite garantizar los servicios esenciales de sanidad educación y protección social cumpliendo con la senda de estabilidad

muy atentamente he tomado nota de sus palabras y en teoría

y digo en teoría fortalecimiento de los servicios públicos de la protección social apoyo a la formación

políticas para estimular la economía productiva y compromiso con el empleo prioridades por cierto pactadas con nosotros y además presupuestadas en el actual presupuesto

ustedes van por otros derroteros cuando hay órdenes verbales las hay

de retención de crédito en los capítulos presupuestarios que afectan a gastos corrientes subvenciones e inversiones cuando gracias a nuestra denuncia el gobierno se decide por fin a activar en dos mil once órdenes económicas de contratación y formación de desempleados en los ayuntamientos pero no de dos mil catorce sino de las aprobadas el año anterior y sin haberse llevado a cabo y que tendrían que ser activadas

en el año dos mil trece y en el año dos mil catorce y cuando en la primera ocasión en que tuvieron la responsabilidad de presentar un proyecto presupuestario de expresar su voluntad económica de su gobierno

en investigación y en promoción económica recortes es verdad corregidos en el presupuesto del dos mil catorce porque actuamos

en los ingresos a través de una reforma fiscal y de un combate contra el fraude que esperemos que dé sus frutos y por eso ahora nos preocupa que usted resucite

de esas de que no podemos gastar lo que no tenemos y nos preocupa que ponga el énfasis en el gasto y no especialmente en la concreción de medidas fiscales de verdad nos preocupa que con la excusa del déficit cero

a asomar la cabeza porque señor lehendakari nos hemos cansado de oírles presentar planes

de proyectos e iniciativas que nunca llegan a materializarse más que y en las televisiones y entonces estamos teniendo la sensación de que vamos a tener que empezar a desconfiar de sus verdaderas intenciones respecto al cumplimiento de los acuerdos y por eso hemos pedido y reitero aquí formalmente la reunión de la comisión de seguimiento para la próxima semana porque sinceramente estamos teniendo muchas
muestras de desconfianza hacia los acuerdos alcanzados con ustedes eskerrik asko pastor jauna lehendakari jauna zurea da hitza

señor pastor están ustedes cansados de los planes que presenta el gobierno bueno pues estén descansados como lo estuvieron en su gobierno que no presentó programa de gobierno

con el cumplimiento de la legalidad y estamos comprometidos con la senda de estabilidad presupuestaria que ustedes junto con el partido popular con la reforma de la constitución nos impusieron no es un capricho es la garantía necesaria para el crecimiento y el empleo

se debe a la servidumbre de la deuda señor pastor sabe de dónde viene esta deuda entre el año dos mil nueve y el año dos mil once

y en realidad gastó cinco mil setecientos treinta millónes el doble la consecuencia la pagamos hoy

ochenta millónes para pagar la deuda este año necesitamos ochocientos millónes señor pastor

hoy las cuentas están saneadas y controladas podemos aspirar a cumplir la senda de estabilidad es una aspiración que genera confianza crecimiento y más ingresos esta es la vía la de los más ingresos y ahora señor pastor quizá comprenda por qué el rating de solvencia de euskadi está volviendo a crecer

una garantía para el compromiso fundamental de este gobierno sanidad educación y protección social esta es la prioridad no coyuntural sino estructural vamos a garantizar los servicios esenciales de hoy y de mañana

eta emateko orduan desde el grupo popular queremos saber qué criterios han seguido en la cobertura de la festividad de san prudencio en la emisión de los dos teleberris

en cuando al seguimiento concreto realizado en e i te be este fue llevado a cabo según los criterios mencionados con anterioridad así el veintisiete de abril la noticia de la festividad de san prudencio fue portada de informativos de e i te be

en el cuerpo del informativo de la noche se ofreció una noticia con los elementos festivos y sociales propios de la festividad alavesa

se ofreció cobertura en los informativos del mediodía y de la noche

por tanto señora garrido aún siendo conscientes de lo difícil que resulta contentar a todas las personas sensibilidades y gustos

usted señora consejera sabe perfectamente cuál fue la cobertura que tubo la festividad de san prudencio y me estoy refiriendo a las dos emisiones del teleberri en euskera y castellano del mediodía

errealitatea guztiz kontrakoa izan zen tanto en el avance como en el bloque informativo de los dos teleberris

nacionales e internacionales y por detrás de aspectos muchos más alejados de la actualidad del momento y de la realidad alavesa y vasca

ere obviaron escondieron los actos centrales de la festividad de san prudencio y me estoy refiriendo a los informativos del día veintiocho y me estoy refiriendo

de oro en varias emisiones ni emitieron declaraciones del diputado general de álava ya sabemos que el lehendakari no estuvo presente en esas festividades

emitieron casualidad las declaraciones de la consejera de interior emisio batzuetan diputatu nagusiaren adierazpenak ere ez ziren

el problema señora consejera comprenderá no es

más o menos el problema es que una vez más se ha hecho un feo a álava y a los alaveses en e i te be el problema es que una vez más

a álava y a los alaveses en la televisión pública vasca berriro araba eta arabarrak alde batera utzi dira euskal telebista

ez da berria pero esto no es nuevo señorea consejera

celebración de la fiesta de la blanca el chupinazo

conmemoraciones también respecto al bicentenario de la batalla de vitoria que ustedes tuvieron que rectificar la cobertura de los partidos

y del alavés la realidad es que una vez más los alaveses nos vemos relegados a la cola del interés informativo que se decide en e i te be

a qué criterios espero que hoy usted en esta tribuna nos despeje de una vez por todas

los alaveses y no me diga que es el mismo tratamiento respecto a otros acontecimientos de otros territorios porque recuerdo y todos

la excelente cobertura que se dio por ejemplo a la tamborrada de san sebastián con un reportaje exclusivo

del tambor de oro y que conste que nos parece muy bien al grupo popular que se

de esa forma la información relativa a una festividad concreta como puede ser

pero lo que exigimos también esa cobertura sea igual

de los territorios y que en definitiva etb sea una televisión pública cercana

la jornada festiva y especial atención merece la cobertura de radio vitoria que llevó a cabo una programación extraordinaria en concreto la siguiente el veintisiete de abril se ofreció en directo la retreta y la tamborrada y el veintiocho de abril se ofreció en directo el tradicional zortziko

y por la tarde se realizó la retrasmisión de la tamborrada infantil y la cobertura de la fiesta de la chocolatada

no es si están más horas o menos horas el problema es cuestión de otro tipo de sensibilidades que usted ha citado
y no precisamente por los alaveses en su conjunto eskerrik asko

buenos días a todas y a todos señor lehendakari conocemos perfectamente las declaraciones racistas del alcalde de sestao

me dan vergüenza pero las conocemos todos y usted también las conoce

racistas y xenófobas el alcalde se permitió decir que incumple frecuentemente la ley dijo que yo la incumplo todos los días y a todas horas

que un alcalde del partido nacionalista vasco diga que incumple la ley todos los días por lo tanto yo le pregunto por las declaraciones que son xenófobas

impresentables e inaceptables y también le pregunto por el hecho de que haya un alcalde del partido nacionalista vasco que diga que incumple la ley considera admisibles las palabras racistas del alcalde

usted ha dicho ya que no son admisibles pero no van a tener ninguna consecuencia no deberían tener alguna consecuencia no cree usted que debería dimitir

no cree usted que si no dimite el partido nacionalista vasco debería expulsarlo no cree que si no dimite y el partido nacionalista vasco no lo expulsa el partido nacionalista vasco estaría admitiendo y dando por buenas unas declaraciones
absolutamente impresentables e inaceptables gracias eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro efectivamente se ha presentado una denuncia en el juzgado es cierto

adelantar un juicio al respecto señor maneiro y esto no tiene nada que ver con unas palabras inapropiadas e inadecuadas en cualquier caso con denuncia o sin denuncia

adierazpenak ez dira egokiak baina ez dira ezta ere arrazistak no hay una actitud racista en las instituciones vascas

gobernadas por el partido nacionalista vasco ni en el ayuntamiento de sestao ni en los partidos políticos representados en el pleno

en las palabras del alcalde así lo han afirmado los colectivos de inmigrantes quienes han aceptado las disculpas y reconocido

así lo han reconocido también las inmobiliarias con las que se reunió el alcalde han confirmado que en ningún momento hubo declaraciones racistas

guztion artean bi gai horiek banatzen ezberdintzen laguntzea delincuencia e inmigración no están unidas señor maneiro

sí gracias señor lehendakari lo nuestro es una denuncia política

y exigimos que esas declaraciones que sí son racistas de este alcalde tengan consecuencias y le pedimos a usted también que le exija al alcalde y que si no lo hace el partido nacionalista vasco debe expulsarlo de su partido político esto es lo que debe hacer las declaraciones del alcalde son

las disculpas posteriores son insuficientes no basta con disculparse sus declaraciones de hoy aquí diciendo que son declaraciones inapropiadas son claramente insuficientes la nota emitida por el partido nacionalista

es claramente insuficiente no basta con decir que fueron unas declaraciones inapropiadas no basta con esto hay que exigirle que dimita y si no dimite el partido nacionalista vasco debe expulsarlo

absolutamente inaceptables y yo le insisto en una cuestión

este alcalde dijo que incumple la ley todos los días qué le parece a usted esto señor lehendakari que haya un alcalde del partido nacionalista vasco que diga que incumple

un representante político lo que debe hacer es cumplir la ley servir a los ciudadanos luchar contra la pobreza luchar contra la desigualdad en lugar de insultar

este alcalde usted debe decir no solo que no está de acuerdo sino que debe impulsar su propia dimisión y su expulsión del partido nacionalista

yo creo que este hombre necesita unas clases particulares de democracia de civismo y de respeto al estado de derecho evidentemente esas clases
no debería darlas el partido nacionalista vasco pero sí que debería pagarlas eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor maneiro yo no sé si usted recibe clases particulares con el sueldo que cobra como parlamentario

en todo caso usted es parlamentario vasco y yo soy lehendakari porque soy parlamentario vasco lo mismo que usted con el añadido de que soy lehendakari usted como parlamentario vasco le ha pedido a su diputado en el congreso de los diputados toni cantó

se retracte de cuantas afirmaciones ha hecho a lo largo de su andadura en el congreso de los diputados

insisto se ha presentado una denuncia en el juzgado y no me corresponde adelantar el juicio al respecto y también digo lo que he dicho antes no tiene nada que ver con unas palabras inapropiadas e inadecuadas en cualquier caso no le parece suficiente que un lehendakari diga

con denuncia o sin denuncia y le repito que los colectivos de inmigrantes han aceptado las explicaciones que las inmobiliarias que se reunieron con el alcalde han hablado de una manipulación es más le leo lo dicho por el sindicato ela del ayuntamiento de sestao sos racismo ha acusado a la policía local de abusos palizas y golpes contra inmigrantes con el fin de presionarles para que acabaran marchándose del municipio exigimos a sos racismo una rectificación pública con el mismo despliegue de medios con el que hicieron estas injuriosas

no hay racismo señor maneiro el problema que afrontamos está muy circunscrito y localizado

incivismo no relacionado con la inmigración sino con la delincuencia señor maneiro este es el problema que nos preocupa y que ocupa no eludimos nuestra responsabilidad el gobierno está comprometido y va a seguir trabajando codo con codo con el ayuntamiento

la atención social y las ayudas para la integración de las personas junto con el ayuntamiento y el alcalde ayudas para favorecer el crecimiento económico y la empleabilidad de las personas
y también colaboración para afrontar los problemas de delincuencia e incivismo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí gracias presidenta señor consejero que creo que es el que me va a responder a esta interpelación la situación

y me refiero a españa una grave crisis económica recortes sociales que perjudican a una mayoría de ciudadanos incremento de la desigualdad

miles de familias sin recursos miles de familias sin prestaciones incremento de la pobreza incremento de eso que se llama la pobreza

infantil nosotros hemos presentado varias iniciativas en el congreso de los diputados para ayudar a salvar esta situación y a dar la vuelta situación tan complicada y tan injusta en fin hay innumerables informes relativos a esta cuestión

en los últimos meses en relación al incremento de la pobreza en el conjunto de españa euskadi no es una isla en euskadi también la situación es muy complicada puede decirse que en distintos aspectos la situación económica de euskadi evidentemente es mejor la mayoría de las comunidades autónomas españolas pero aquí también hay desempleo que se incrementa constantemente aquí también hay desigualdad aquí también hay pobreza aquí también hay pobreza infantil tenemos el sistema

y luchar contra esa pobreza pero se está demostrando que está siendo insuficiente está siendo insuficiente y por lo tanto el gobierno

de desigualdad y de pobreza específicamente de pobreza y en concreto de pobreza infantil lo cierto es que el pasado día diecinueve

ya prácticamente diez meses nosotros presentamos una iniciativa en este parlamento en la que pedíamos al gobierno medidas concretas para luchar contra

en aquella intervención en aquel debate explicábamos los datos recogidos en el primer estudio monográfico realizado en el país vasco sobre pobreza infantil un estudio que destacaba que la pobreza infantil en euskadi

de catorce años el once coma ocho por ciento de la población en esa edad los cuales viven en una situación de riesgo de pobreza de mantenimiento esto es de verse privados de lo más básico a lo largo del tiempo ese estudio alertaba de que se están produciendo

los mayores de sesenta y cinco años representaban el veintisiete por ciento de todas las personas en situación de pobreza en la comunidad autónoma mientras que ahora suponen el doce por ciento su sitio ha sido ocupado por los niños en el mismo periodo de tiempo ha pasado de ser el catorce por ciento de los pobres

actual y los menores de treinta y cinco años ya superan el cincuenta por ciento quienes se llevan la peor parte son los niños pertenecientes a familias

obviamente como decía antes el sistema vasco de protección social supone un dique de contención al incremento de la pobreza pero en todo caso no está siendo suficiente la situación es muy grave y se agrava año a año

en los últimos meses las conclusiones del informe comienzan diciendo que en europa la pobreza infantil se considera no solo como un atentado

seria a la equidad y a la cohesión social las estadísticas dicen que desde dos mil cuatro está creciendo fuertemente las situaciones de pobreza infantil

un treinta por ciento que se eleva más en este grupo de población que en el resto que los más desfavorecidos pertenecen a familias inmigrantes monoparentales y numerosas que estos niños en ausencia de bienestar tienen el doble de problemas escolares que el resto que el nueve por ciento de ellos tienen riesgo de sufrir maltrato acoso

dice el informe que estos indicadores justifican sin duda la necesidad de adoptar políticas

en esta cuestión tal y como han hecho la mayor parte de los países de nuestro entorno ya digo que el sistema vasco de protección social es un dique importante para luchar contra esta situaciones pero está siendo claramente

lo cierto es que meses después de presentar esta iniciativa parlamentaria en cuanto se puso en marcha el parlamento

esta iniciativa y el día dieciséis de octubre del año dos mil trece hace ya más de seis meses se aprobó una enmienda transaccional en la comisión correspondiente

al gobierno vasco a elaborar e impulsar en colaboración con las diputaciones forales y los ayuntamientos de euskadi y en el plazo máximo de cuatro meses un plan que recoja las medidas necesarias para hacer frente a la pobreza y la exclusión social

medidas específicas dirigidas a la prevención y lucha contra la pobreza infantil se instaba también al gobierno vasco a que una vez elaborado el plan y aprobado en el consejo de gobierno se presente para su debate ante la comisión de empleo sociales yo le pregunto señor consejero por este plan cuándo vamos a tenerlo aquí para que podamos debatirlo y entre todos los grupos intentemos aportar lo mejor de nosotros para tener el mejor plan posible que haga frente

de elaborar e impulsar un plan interinstitucional que recoja medidas para hacer frente a la pobreza y la exclusión social contemplando especialmente medidas específicas para prevenir la pobreza infantil

ha sido la de evaluar la situación actual asumiendo que cualquier actuación en esta materia exige plazos mucho más dilatados de los previstos en el acuerdo de esta cámara

que a su vez está relacionada con la situación económica general con la posibilidad de acceso a un empleo y con unos recursos económicos suficientes

del contexto general de crisis económica el acuerdo del parlamento coincide con otras dos iniciativas que actualmente está desarrollando el departamento de empleo y políticas sociales la primera de gran calado la redacción de un nuevo plan de inclusión activa

la segunda es la revisión de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales

hemos decidido adelantarla dos años para tener un conocimiento más cercano más real de la situación actual

nos permitirán tener una imagen mucho más completa y certera de dónde estamos y cómo se pueden abordar las necesidades actuales de las personas en situación de pobreza somos conscientes de

debe realizarse desde las situaciones más graves y más urgentes hasta recalar

las relativas a situaciones de pobreza estructural de acumulación el informe de pobreza infantil de euskadi reconoce que la pobreza se ha atendido

de forma modélica y como asunto prioritario en la comunidad autónoma la pobreza de la población infantil es una derivada de aquella trazado el umbral de la pobreza en función de la situación del conjunto de la población

y también hay familias que se sitúan por debajo se trace donde se trace hay una realidad evidente hay familias con menores que pasan dificultades para sostener un nivel de vida suficiente y esto habrá que tenerlo en cuenta en el futuro la profundidad y duración de esta crisis ha incorporado esta cuestión a la agenda política y social como apartado específico se ha visibilizado esta realidad

que subyacen a este tipo de situaciones y sobre todo estamos estudiando cómo contribuir a la mejora de las políticas públicas que se desarrollan en relación a las familias con menores y especialmente a las familias que están en situación de pobreza de forma más concreta

ha elaborado un plan de trabajo que incluye medidas que ya se habían iniciado con la revisión del plan de inclusión activa y otras a raíz del acuerdo del parlamento sobre esta materia

que sea capaz de erradicar la pobreza en cuatro meses tenga la voluntad y los recursos que tenga hasta el momento las actuaciones realizadas son las siguientes

el plan vasco de inclusión activa y que ya se están desarrollando abordan directamente las situaciones de pobreza infantil esta labor ya está realizada y además se ha contrastado

también el diseño de un cuadro general de posibles medidas que deberían adoptarse y los pasos que supondrían porque muchas de estas medidas exigirían cambios normativos

e incluso a otras instituciones este cuadro podría comportar

de urgencia y tampoco del mismo nivel de dificultad de hecho se baraja alguna modificación reglamentaria que hoy por hoy

aceptando los principios normativos de superior del niño de su no discriminación

de todas sus potencialidades y de sus derechos a la educación y la participación constatamos que es difícil deslindar la pobreza infantil

más que de niños y niñas pobres estaríamos hablando señor maneiro de familias pobres y fundamentalmente de padres y madres que perciben ingresos insuficientes para mantener unos niveles de vida mínimos para ellos y para sus hijos e hijas luego la cuestión relevante no se refiere tanto a la pobreza infantil

y por tanto a la insuficiencia de los ingresos de sus padres y madres poner un énfasis excesivo en la pobreza infantil implica

ahora bien dicho lo anterior no elude reconocer la necesidad de desarrollar políticas específicamente dirigidas y centradas en la prevención y en el tratamiento de la pobreza infantil tanto en lo que se refiere a reducir la incidencia de la pobreza entre las familias con hijos e hijas

y en las perspectivas de futuro de los niños y niñas que se encuentran en esa situación mediante la prestación de medidas compensatorias y de los apoyos sociales y socioeducativos que resulten adecuados por todo ello creemos que es importante definir y hacer un seguimiento de la pobreza infantil para hacerla visible y abordar la cuestión con ciertas garantías la infancia no debe ser tratada como mera subsidiaria de la acción familiar exige más proactividad y prevención los servicios públicos y la responsabilidad pública deben anteponer las condiciones de vida de los niños y niñas sobre cualquier otra consideración la estrategia para afrontar la pobreza infantil ha de ser integral y de carácter universal

en los ámbitos en los que los menores desarrollan su actividad vital en el sistema educativo el sanitario

en el ocio debe establecer sistemas de detección de intervención de prevención medidas que van desde el empleo de los padres hasta las ayudas económicas a las unidades familiares complementadas con medidas de largo plazo como la atención infantil y la intervención precoz

el dinero en esto es importante siempre lo es y por ello es preciso prever a futuro medidas económicas cuando las condiciones permitan mejoras

el desarrollo de los servicios de atención infantil y la prestación de apoyos a los padres y madres para poder ofrecer a sus hijos e hijas un contexto educativo y afectivo adecuado

y siempre con la colaboración de las instituciones competentes sería necesario indagar qué tipos de prestaciones de apoyo a las familias pudieran llegar a implementarse a través de políticas de otro tipo este tipo de prestaciones simplifican el sistema

la estigmatización y contribuyen a devolver al empleo su capacidad

el empleo es importante y aun cuando la empleabilidad de los progenitores sea la garantía por excelencia para afrontar la pobreza infantil en caso de dificultad laboral

que no estén basados en el empleo es esencial el papel de la escuela en el combate de la pobreza infantil porque puede contrarrestar el impacto de la desigualdad de los contextos familiares puede incrementar el esfuerzo orientado al alumnado más desfavorecido y reforzar los apoyos escolares específicamente orientados a estos alumnos desde ese punto de vista además de agentes de igualdad los centros educativos son focos privilegiados

estas intervenciones en clave selectiva y de discriminación positiva

orientados al conjunto de la población pero preferentemente ubicados en aquellos barrios más desfavorecidos

accesibles a las personas con menores recursos si bien tales recursos deben estar orientados al conjunto de la población infantil su ubicación programación

al trabajo con los niños y niñas que tienen que soportan mayores dificultades como he señalado

excede de las competencias de este departamento de empleo y políticas sociales implica al conjunto del marco institucional de euskadi y requiere un horizonte temporal más extenso con respecto al departamento de empleo y políticas sociales tal y como hemos explicado anteriormente las acciones previstas

que estamos trabajando con los agentes sociales con los agentes del tercer sector en el plan de inclusión activa que será presentado en los próximos meses y que debieran incluir materias como las siguientes en primer lugar una revisión de la normativa referente a la renta de garantía de ingresos una revisión que pueda incidir en una mejora diferencial

con menores a cargo en segundo lugar una revisión de los diferentes sistemas de ayudas sociales y su posible refundación en una única en tercer lugar una revisión de las ayudas familiares

y finalmente la realización de campañas de formación y sensibilización para facilitar a los y las profesionales que trabajan con menores la detección de situaciones de necesidad derivadas de la falta de recursos en este tipo de familias

sí gracias señor consejero lo importante es que ustedes tomen conciencia del asunto y cuanto antes actúen en fin o se siga actuando o entre todos sigamos actuando o que entre todos seamos capaces de poner sobre la mesa medidas concretas

contra esta lacra que lo tengan presente que sea un asunto relevante para el gobierno que no sea un tema

que le dediquen una gran atención esto es lo que a nosotros

lo fundamental evidentemente compartimos que la situación

y la situación de pobreza infantil y el incremento de estas situaciones en los últimos meses en los últimos años es consecuencia de la crisis económica y de los recortes sociales que se han impulsado y de determinadas medidas que no se han terminado poniendo en marcha

cambiar esas políticas económicas para intentar crear riqueza acabar con las desigualdades crear empleo y a partir de ahí salir de esta situación

familias pobres no logra acceder a las ayudas sociales

el seis coma dos por ciento de los hogares vascos con niños vive en la pobreza radical aumentan los hogares vascos que no pueden llegar

el doce coma tres por ciento y ese nuevo modelo que consiste en que hay personas hay ciudadanos que trabajan y sin embargo a pesar de que trabajan y como consecuencia de la precariedad laboral de los bajos sueldos ni siquiera pueden llegar por lo tanto actuaciones globales que efectivamente corresponden no solamente al gobierno vasco sino al conjunto de las instituciones vascas y más allá

el gobierno vasco evidentemente el gobierno de españa también podría hacer muchísimo más

de actuaciones que deben ponerse en marcha y que deberían haberse puesto en marcha ya y en concreto nosotros lo que pedíamos a través de esa transaccional

en marcha de un conjunto de medidas específicas para luchar contra la pobreza y contra la exclusión social fueran también medidas específicas dirigidas a la prevención y lucha contra la pobreza infantil esto fue lo que se aprobó en este parlamento hace más de seis meses se pedía este plan

no ha presentado este plan creo que este plan debería presentarlo el gobierno más allá de que vaya realizando efectivamente otro tipo de actuaciones en este

en fin una serie de medidas que podían ponerse en marcha elaboración a nivel de euskadi de una estrategia o plan de intervención de carácter integral e interinstitucional para la prevención y el abordaje de la pobreza infantil dar a la pobreza infantil un carácter prioritario a corto plazo

las cuantías de la renta de garantía de ingresos de forma que se considere en mayor medida el tamaño familiar a medio plazo

a las familias con hijos e hijas reforzar la dotación de centros de atención infantil y las ayudas económicas para el acceso a tales centros

reforzar los servicios de apoyo especialmente en el ámbito sanitario y escolar para garantizar su universalidad real impulsar programas de intervención comunitaria

de equipamientos comunitarios en fin un cúmulo de ideas que nosotros consideramos apropiadas en todo caso nosotros queremos que el gobierno actúe que se tome este asunto

cuanto antes se pongan en marcha estas medidas y este problema que es de primera magnitud no se considere por el gobierno como un problema menor

cuando se sientan una serie de expresiones que sirven para generar incertidumbre yo creo que debiéramos pensarlas un poco más cuando se dice

parece que se está diciendo que no se lo toma en serio y usted sabe que eso no es verdad y usted sabe que

mire tenemos un sistema de protección social modélico

si en términos relativos lo comparamos con lo que ocurre en países de nuestro entorno europeo desde los trescientos tres euros de las prestaciones

pasando por los trescientos noventa y uno del regelsatz alemán o por los cuatrocientos noventa y nueve

esa es la realidad seiscientos dieciséis euros en euskadi

sabe usted señor maneiro cuánto se gasta euskadi en rentas de garantía de ingresos y ayudas de emergencia social y cuando digo que se lo gasta euskadi es porque tenemos un sistema de protección social que hemos construido entre todos

el cuarenta y uno coma seis por ciento del gasto en ese tipo de materias

se realiza en esta comunidad autónoma no creo que en porcentajes de población seamos lo mismo frente al quince coma cinco por ciento que gasta cataluña

compare usted los términos simplemente comparativos de carácter poblacional creo que es importante poner en valor lo que tenemos y eso es lo que voy a pretender hacer en esta última intervención sin desdeñar que la pobreza infantil es un elemento que debe ser tenido en cuenta y que una de las medidas parte de haber limitado las cuantías máximas de la rgi a aquellas familias con tres hijos a partir de ese momento

traeremos las medidas en el plan de inclusión activa siendo responsables también señor maneiro con los recursos de los que disponemos mire

seamos conscientes todos de cuál es la realidad en la que estamos tres gráficos sencillos el primero de ellos hace referencia

la relación entre el gasto y la población beneficiaria de este tipo de ayudas en euskadi gastamos

por persona en españa cuatrocientos setenta y cinco euros hay que multiplicar por veinte señor maneiro para que la media española

esta es la realidad señor maneiro sabe cuál es la tasa de cobertura usted decía una de cada cuatro familias está en situación de pobreza y que no llega a percibir ayudas sociales sabe cuál es la tasa de cobertura en estos momentos en euskadi de las personas que resultan beneficiarias y que están en situación de riesgo de pobreza

el setenta y ocho por ciento sabe dónde está españa

que dentro de la media española está euskadi con ese setenta y ocho por ciento

en qué situación estamos sabe cuál es el porcentaje del pib que nos gastamos en rentas de inserción

el cero coma sesenta y dos aquí está euskadi y aquí está españa

para llegar a una tasa del cero coma sesenta y tres usted no cree señor maneiro que euskadi es una isla

y ojalá no lo fuera tenemos margen de mejora tenemos que llegar

pero usted sabe igual que yo que en materia de protección social en materia de asistencia social las necesidades siempre van a superar a nuestras posibilidades de actuación tenemos que ser lo más eficaces posibles para atender a que fluyan en una misma dirección

siempre partiendo del sistema que tenemos que ha sido insisto creado entre todos y que creo que es necesario

adaptando perfeccionando en virtud de las eventuales variaciones que se produzcan en función de las nuevas necesidades y se configura de forma que sea posible la adecuación incorporación

fecha aproximada de su presentación en el consejo de gobierno hori

nosotros traeremos a esta cámara la proposición de ley de la legislación sic de la cooperación

de la ley de transparencia la ley de las iniciativas legislativas populares el deporte la ley de la consulta la de la protección de la naturaleza la de los puertos

señora presidenta buenos días señoras y señores parlamentarios

sobre una posible contradicción de intereses y la reflexión que sobre ello realiza el gobierno vasco y en este caso

ha quedado claro que pueden plantearse intereses contradictorios en el desempeño de funciones públicas y privadas dentro del ejercicio de responsabilidades

defender los intereses de itzarri epsv entidad privada inversora en tubacex en la presidencia de los órganos de gobierno en la presidencia de

está claro que es distinto a defender los intereses de la política

y a trabajar porque las inversiones de las empresas vascas se queden en euskadi

manifiesto en dos comparecencias en esta cámara de distintos miembros del gobierno el asunto de tubacex y su inversión fuera del país vasco y por otro lado los intereses económicos de itzarri epsv

situación contradictoria en relación con las decisiones y con las posiciones de los dos ámbitos en los que se mueve su actividad esa

y en ese sentido ya tuvimos una reflexión también en comisión pero yo creo que es bueno después de esa apelación

en lo relativo a la defensa de la política del gobierno

y por otro lado de los intereses de itzarri epsv desde la presidencia de la

barrio no busque contradicciones donde no las hay le pido que no las busque la defensa de estos dos intereses que usted ha manifestado y son intereses que respalda el gobierno es compatible y se refuerza entre sí tubacex

el gobierno mantiene una relación permanente y constructiva con la empresa de la que yo puedo dar fe personalmente incluso

de la consejera de desarrollo económico y competitividad tubacex en la última década ha realizado inversiones por más de cien millónes de euros y esta semana hemos leído en los medios de comunicación hemos visto en los medios de comunicación esta semana ha anunciado nuevas inversiones
por treinta millónes garantizando la presencia de su actividad y centro de decisión en euskadi isiltasuna mesedez donde cuenta con mil trabajadores

es razonable que esta empresa que está internacionalizada

el fondo de pensiones itzarri por otra parte ha apostado por participar en la empresa tubacex y esta es una participación de las funcionarias y de los funcionarios del gobierno

de la epsv sea el consejero de administración pública y justicia yo considero coherente y considero positivo que las entidades de previsión social de euskadi

equiparables a cualquier inversión en el mundo señor barrio el gobierno vasco apoya a las empresas y su competitividad defendemos los intereses de euskadi

como insisto que es tubacex significa que las empresas toman decisiones de inversión

internacionalizadas también lógicamente invierten fuera pero manteniendo aquí sus centros de decisión y su compromiso con las mayores inversiones aquí como se ha demostrado

porque el gobierno vasco la primera reacción en relación con la inversión fuera de euskadi de tubacex fue sentirse molesto y decepcionado lo conocemos porque fue público al gobierno vasco la decisión de tubacex

y de invertir y en palabras de la señora consejera es evidente que no os ha gustado ni en el fondo ni en las formas eso lo ha dicho y eso se lo hemos oído y

una contradicción de intereses que bien podría ser más grave

en este caso nos parece bastante poco estético

erkoreka en su comparecencia ha preguntado sobre esa compatibilidad o incompatibilidad en relación con sus funciones públicas y privadas

yo le puedo asegurar que en ningún momento le pedí que se me designara presidente de la junta de gobierno

ahí está que hable de esa reflexión yo creo que es importante

el señor erkoreka por un lado

en la comisión donde fue preguntado sobre esta cuestión tuvo que compartir la política industrial del gobierno y tuvo que hacer suyas las palabras de la señora tapia

es decir comparte usted la decisión de itzarri de invertir en cantabria

comparte que itzarri tome esas decisiones en relación con tubacex pues tuvo que decir que sí es decir hay una contradicción de intereses señor

lo han hecho así y yo insisto en la relación que mantenemos con la empresa yo mismo manifesté mi sorpresa y mi malestar por las formas utilizadas por tubacex para anunciar una inversión fuera de euskadi después de que nosotros mismos la consejera y yo mismo hubiéramos estado reunidos con el consejo de administración

esta es la realidad pero a partir de ahí ahora utilizan también la decisión de una entidad

señor barrio no ha dicho otra cosa más que que habrá que ver los resultados esto es lo que ha dicho el consejero de administración pública y justicia y presidente de la entidad de previsión ustedes no plantean alternativas no

cuando no hay razón para una diferencia entre tubacex como empresa y el gobierno vasco y la decisión de los funcionarios y funcionarias del gobierno vasco que tengan sus ahorros en esa entidad de previsión social los datos objetivos señor barrio no avalan su posición
tubacex sigue invirtiendo isiltasuna mesedez y sigue confiando en euskadi y creo que es una buena noticia
sigue invirtiendo en las empresas vascas y obteniendo una rentabilidad por estas inversiones y creo que es una buena noticia lo relevante señor barrio es que euskadi sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera le recuerdo que por mucho alarmismo y dramatismo que se pueda interpretar en esta tribuna los datos confirman la confianza en euskadi y sin ir

a preguntas que ha habido anteriormente también lo que sí le digo es señor barrio es que gracias al atractivo y a la solvencia de este país

y yo alabo lo que los ciudadanos y ciudadanas

usted votó a favor del derecho a la autodeterminación de euskal herria hace un mes usted mismo nos recomendó a los miembros de la ponencia de autogobierno

que aparcáramos el debate sobre el derecho a decidir eufemismo del derecho a la autodeterminación cuatro días después de aquellas declaraciones suyas el señor le respondía en esa ponencia se hablará de todo también a decidir en los últimos tiempos ustedes han hablado de nuevo estatus político para euskadi de nación vasca en europa de actualización del autogobierno dentro de los marcos legales establecidos señor lehendakari qué futuro quiere para euskadi debe aclararlo qué modelo

en qué modelo de estado usted se sentiría cómodo si es que se sentiría cómodo en algún tipo de modelo de estado en un estado federal asimétrico en un estado confederal que no existe en ninguna parte del mundo o no quiere formar parte de ese estado o quiere la independencia

usted señor lehendakari la independencia de euskadi cómo piensa lograr este objetivo con quién cómo cuándo pretende arrastrar a euskadi al enfrentamiento con el resto del país

supongo que se refiere al estado español y en relación a euskadi la apuesta es un nuevo modelo de relación entre euskadi y el estado que partiendo de las propias potencialidades contempladas en la disposición adicional primera de la constitución y en el estatuto debía

y más avanzado basado en los siguientes principios que como lehendakari defiendo bilateralidad efectiva más

como una de las opciones contempladas también en la proposición no de ley aprobada ayer

voz propia en europa un desarrollo integro del autogobierno que insisto

la imposibilidad de modificación unilateral del mismo respeto a las decisiones democráticas adoptadas por el parlamento y ratificación mediante la consulta legal y pactada estos principios son la base

de la que tantas veces le he respondido en relación a otras cuestiones

a que se la lea tanto en este documento de octubre de dos mil cinco

propongo un nuevo modelo de estado abierto a un diálogo cuyo resultado no esté predeterminado que desde la lealtad mutua y la negociación de buena fe pueda dar cauce a todas las aspiraciones políticas que se planteen de forma democrática

en este parlamento se ha creado una ponencia a iniciativa del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi que creo que debe convertirse en un crisol de encuentro

y yo le digo que no cierra nada sino que abre el mismo texto aprobado ayer es de aplicación a la aprobación

es que no se ha cumplido y sigue sin cumplirse y ahora tenemos la oportunidad de aprobar un nuevo marco desde el diálogo negociación acuerdo y ratificación

gracias lehendakari cómo pretende alcanzar esos objetivos

con quién pretende negociar quién cree que le va a acompañar en ese viaje quién cree que le puede dar la razón el partido popular el partido socialista la constitución española

que pueden cambiarse señor lehendakari pueden cambiarse a través de los procedimientos legales establecidos usted esto tiene claro

los procedimientos establecidos para llevar a cabo cualquier tipo de modificación de cualquier ley y en concreto la modificación de la constitución española

que la constitución española puede cambiarse por lo tanto pero a través de estos procedimientos tenga en cuenta

lo decidimos todos los españoles no olvide que el derecho a decidir corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles tiene usted esto claro señor lehendakari tenga claro también que upyd

a cualquier tipo de reforma que implique más desigualdad que implique la ruptura del país o que implique el levantamiento de nuevas fronteras interiores tanto aquí

y que vamos a abogar justo por lo contrario en la medida de nuestras fuerzas que son cada vez mayores vamos a defender más unión más igualdad

a los propósitos del nacionalismo y en particular del nacionalismo vasco que siempre opta por más ruptura y más división

señor lehendakari todas estas cuestiones porque son importantes

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro nos encontramos aquí tenemos una oportunidad que nunca hemos tenido y le reitero una vez más que este es el parlamento en el que los proyectos deben ser planteados debatidos y decididos usted defiende

y otros defendemos otros planteamientos son diferentes lo relevante es que todos los proyectos puedan ser defendidos y satisfechos en función de las mayorías que existan ya usted ha definido

déjenos a los demás que tenemos nuestro proyecto intentar buscar consensos diálogo negociación acuerdo y ratificación este es el procedimiento que quiero seguir

pero algo ha cambiado qué ha cambiado la evidencia de que el modelo actual no responde satisfactoriamente a las demandas y aspiraciones que se están planteando

el análisis comparado de los resultados electorales de este pasado domingo es

de una realidad nacional diferenciada y esta realidad

o se puede aceptar y el nuevo modelo de estado que propongo asume esta realidad no la niega señor maneiro eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lehendakari consejeros señorías no fue el día nueve sino el día siete cuando a petición del grupo socialista compareció el consejero de empleo políticas sociales y vivienda el señor aburto en comisión para hablar

planteó que veía el horizonte del mes de junio para concluir el mismo y en la comparecencia del día doce del señor erkoreka de función pública que planteaba que ese horizonte no sería sino que sería en otro momento ante la evidente contradicción el señor erkoreka

el señor aburto no había fijado taxativamente que fuera junio sino que era

pero lo que sí dijo de forma muy clara es que mientras no se realice la relación de puestos de trabajo de lanbide todo el edificio se caería es decir

de las políticas de empleo se verían arrumbadas mientras no se realice la relación de puestos de trabajo es por esta razón señor lehendakari

el servicio de lanbide si no se aprueba esa relación de puestos de trabajo en el mes de junio

eskerrik asko mahaiburu andrea señor itxaso nuevamente hablamos de la rpt de lanbide creo que la

no solamente comparecí yo mismo compareció el consejero erkoreka pero es que previamente ya había comparecido el director general de lanbide no le voy a aceptar señor itxaso que en la justificación que por escrito constaba bien es cierto que en su manifestación actual ha matizado algunas de las cuestiones

en mi boca cosas que yo no he dicho en ningún momento he dicho que la rpt de lanbide habría de aprobarse en junio

la trascripción y que en caso contrario se caería todo el edificio de lanbide la unión de estas dos frases la ha compuesto usted para crear un imaginario y ahora nos pide que demos cuentas por una realidad que no existe que no es tal por lo tanto la rpt de lanbide cuanto antes

si usted analiza las intervenciones del señor erkoreka y la mía propia no hay ninguna contradicción entre las mismas nada más eskerrik asko aburto jauna itxaso jauna zurea da hitza

sí señor aburto claro que ha habido muchas comparecencia a petición nuestra precisamente para esclarecer cuál es el horizonte

para saber cuándo se va a concluir esa labor que ha quedado también reconocida por usted mismo como que es fundamental para llevar a cabo el plan estratégico de lanbide y por lo tanto

lo que es grave es que haya indefinición que es lo que ocurre en este momento porque a día de hoy el gobierno no nos sitúa todavía un horizonte temporal para la conclusión de esa rpt

la idea de que es decisiva de que es importante de que es trascendente la conclusión de ese expediente para poner en marcha efectivamente ese servicio vasco de empleo ágil

pero es que estamos viendo que todo lo que tiene que ver con políticas de empleo incluso las cuestiones que ustedes planteaban en su propio programa no se están cumpliendo están retrasándose de forma en fin yo creo que más que

y le puedo poner muchos ejemplos pero en este trámite no tengo tiempo para ello el señor erkoreka ya se había comprometido a concluir

ustedes planteaban también el diálogo social eso ha caído el fondo de solidaridad por el empleo también ha caído es decir esas cosas

dependen de una acción de gobierno decidida que no estamos viendo por ningún lado y este asunto que traemos hoy aquí no es para apreciar contradicciones es para intentar saber en que horizonte nos estamos moviendo para cuándo se va a concluir

lo que queremos saber es si hay alguna idea de todo eso o simplemente el gobierno anda sin saber cuándo va a concluir ese camino esperando que algún día lo haga

supeditada al albur de las circunstancias tiene que haber objetivos tiene que haber en fin concreción por lo menos aspiraciones de llevar a cabo una acción tan importante y tan trascendente como esta llevarla a término en algún momento no dejar que eso ocurra por el mero transcurso del tiempo eso es lo que estamos inquiriendo en este momento señor aburto nada más y muchas gracias

oyendo esta última intervención señor itxaso tengo la impresión

de otro montón de cosas que tienen muy poco que ver con ese asunto en todo caso ya me hubiera gustado a mí que la rpt cuando llegó este gobierno estuviera hecha que era lo que tenía que haber ocurrido esa era la realidad

y no estaba hecha yo le garantizo que este gobierno va a llevar adelante la rpt entre otras cosas porque no hay otro remedio porque hay que hacerlo porque es un instrumento

al inicio de mi intervención dije por ser lo más directo posible antes de desarrollar mi intervención la aprobación de la relación de puestos de trabajo de lanbide es fundamental

nuestro planteamiento el que yo les había contado anteriormente perdería sentido por lo tanto mejor hoy que mañana mejor mañana que pasado para nosotros es urgente

porque nos estamos jugando el futuro de lanbide porque los conflictos que estamos viviendo en lanbide son conflictos no deseados y también le dije sobre el horizonte temporal

porque quien tiene como decíamos la facultad de negociar es el departamento de administración pública y justicia y el consejero erkoreka dije desde luego contará con toda mi colaboración

aprobar la rpt y dije luego yo me atrevería a decir que a mí desde luego

estuviera aprobado a mí me gustaría eso eso dije y finalmente dije que me preguntó por qué hablé de junio dije que lo que quería decir es y me gustaría trasladarles esta idea que somos los primeros interesados

no vamos a hacer bien las cosas que sin la rpt no estamos haciendo del todo bien las cosas y la rpt nos va a ofrecer oportunidades para actuar de mejor manera pero en todo caso yo le transmito que como usted bien sabe

a día de hoy de lanbide son mejores y eso es bueno para todos sobre todo para las personas que necesitan

o una orientación para el empleo nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako

señor matute estamos demostrando que es posible garantizar los servicios esenciales de salud educación y protección social y es posible a pesar de que tengamos que con la obligación del déficit y es posible porque son la prioridad a la que destinamos más del setenta por ciento de nuestros recursos este es el compromiso con las personas compatible con las inversiones y con las políticas de estímulo de crecimiento y de empleo beraz erakunde publiko askok gaur jasaten duten

que los servicios sociales se garantizan pero es que las cifras no dicen eso es que sus consejeros en alguna ocasión han tenido que reconocer las limitaciones de las políticas públicas que se están poniendo a cabo por efecto de la limitación del o por la ley que nos impusieron usted mismo ha reconocido que nos impusieron

usted parece considerar adecuada nosotros no y lo digo porque el consejero de empleo en alguna ocasión ha reconocido que la renta de garantía de ingresos o que las previsiones de

eso no es un elemento criticable lo que parece criticable es que se diga que se sostiene la protección social cuando se ve que las cantidades asignadas son cortas pero no se trata tampoco de una confrontación en base a lo que yo pienso o lo que usted piense porque por desgracia la realidad nos afea la conducta a todos y a todas

que cuando usted accedió a la lehendakaritza y probablemente no es imputable toda la responsable a usted no lo estoy diciendo así pero sí es cierto que hay doscientos treinta mil personas en riesgo de pobreza y no lo dice eh bildu demasiadas instituciones demasiadas como para no tenerlo en cuenta y ante esa realidad usted nos dibuja un escenario en el que parece que las prestaciones sociales que la protección social se le garantiza a todo el mundo y no es cierto

sabe cuando recurre a los servicios públicos que la atención cada vez es peor que los servicios sanitarios cada vez están más colapsados que las urgencias están colapsadas que la educación y los ratios de profesor alumno empeoran más la calidad educativa todo eso es cierto y sin embargo usted nos sigue dibujando una realidad compatible la de la garantía de la permanencia del estado del bienestar

usted señalaba en campaña electoral y fuera de ella que hacía falta más fuera de ella es decir los días posteriores que en la campaña que hacía falta otra europa es probable

y seguramente sería importante que no haríamos seguidísimos acríticos de las políticas del déficit cero que por cierto son el dogma máximo neoliberal

es que nos hemos endeudado durante unos años de manera impuesta o no pero nos hemos endeudado para saldar la deuda

y por ellos nos estamos endeudando y pagando todos y todas y cuando la deuda se salde que dudo que sea en el dos mil diecisiete

los servicios sociales básicos nos endeudamos por los bancos no lo haremos por las personas esa es la realidad y mientras tanto seguiremos haciendo loas a los empresarios

sin tener en cuenta que quien más extorsiona en este país los derechos sociales y laborales

esa es la lectura que había que entender no otras lo demás es desviar el foco de atención

el rigor y la estabilidad de las cuentas públicas son una garantía lo he dicho

de asignación de recursos y esta es la base para garantizar la confianza en la inversión el crecimiento y la generación de empleo

están saneadas y están controladas cumplimos el objetivo de déficit y esta es una noticia positiva

en lo importante en lo que es el compromiso con las personas yo no me he fijado cuando ha intervenido el consejero aburto en una pregunta anterior si usted estaba presente

pero creo que las explicaciones ofrecidas por el consejero aburto son suficientemente significativas además de explicativas indicativas de lo que es la realidad vasca mire en cuanto a lo que es la atención desde el gobierno vasco le puede indicar también el riesgo de pobreza que existe en euskadi está en una media del diez por ciento cuando el riesgo de pobreza en el conjunto del estado español del que formamos parte también en la comunidad autónoma del país vasco euskadi está en el veinte coma cuatro por ciento

esta garantía hoy en el rigor que nosotros estamos estableciendo se está produciendo ya además un cambio de tendencia positiva positivo en el crecimiento de la economía vasca

vamos a consolidar el crecimiento también del empleo agradezco que no nos impute a nosotros lo que es el crecimiento en el desempleo cuando yo mismo advertí desde el primer día que dos mil trece dos mil catorce iban a ser años muy duros yo mismo advertí que en el año dos mil catorce no íbamos a generar empleo neto estas son mis palabras y esta senda de estabilidad a la que me refiero y crecimiento es la base sólida

esta es la senda y no la que hemos conocido en épocas recientes con un déficit desbocado que no ha supuesto en ningún caso la creación de oportunidades de empleo

eskerrik asko presidente andrea voy a tener yo la capacidad esa de mutación real

pues yo deseo que no se entere por los periódicos de lo que va a pasar finalmente como suele ser costumbre en el estado español lo de enterarse por los periódicos de lo que se hacía en los tiempos de la acción de gobierno de uno o de una porque lo que parece real

no van a servir para nada porque ese viaducto conectaba la necesidad de perforar malmasín con un coste muy importante en millónes de euros

el acceso natural y que venía avalado o sostenido por el pelotazo inmobiliario

porque adif se está replanteando los proyectos se decide hacer a finales del dos mil once

se decide hacer un desvío que llaman provisional pero que ya algunas fuentes señalan como definitivo

sino que va aprovechar la red existente de renfe qué significa eso pues que ha habido

en concreto esta esto esta oda al cemento

estulticia y a la mala gestión y a la mala praxis

que se va a mantener ahí de por vida y esto es triste porque yo creo que esto no es solo el ejemplo más palmario y más doloroso del sobrecoste y de la corruptela que acompaña

pueda estar salpicando a euskal herria a través del tren de alta velocidad es también el ejemplo más claro de lo que significa la ineficacia política porque han plantado

destrozando parte de nuestro medio ambiente para nada pero han permitido que se siguiera haciendo para que las empresas se siguieran enriqueciendo un presupuesto de ocho millónes que se eleva a once sobrecoste notable para algo que no tenía sentido y se sabía desde hace dos años cuando se estaba construyendo y sin embargo nadie ha dicho nada por eso le decía

si acaso que me diga que quizás en un futuro dentro de unas décadas vaya a tener algún uso porque eso por lo menos nos permitiría jugar con el tiempo nos permitiría

usted tenía razón o la teníamos nosotros y nosotras pero no me dice que todo va como tenía que ir yo si me la acepta y si no pues no me atrevería a hacerle una sugerencia

háganlo porque probablemente de algunas de ellas ustedes no tengan ninguna responsabilidad porque si no lo hacen ustedes estarán colaborando de la ocultación a la ciudadanía de un despilfarro público mayúsculo el mayor despilfarro público de dinero público del de todos y todas que se está destinando en este caso al tren de alta velocidad

cómo nos tenemos que apretar el cinturón para poder cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas y mientras tanto seguimos
generando monumentos como este igual acompañará a la central de lemoiz en esa especie de eskerrik asko matute jauna eskerrik asko

muchísimas gracias presidenta señorías muy buenos días lehendakari buenos días consejeros

entre retirar o no la pregunta desde que ayer en vísperas de que usted tuviera que dar explicaciones a esta cámara conocimos que efectivamente se habían pagado algunas cantidades pendientes a los abogados del turno de oficio por un periodista de el país al que de paso le agradezco su interés nos hemos enterado esta mañana hemos conocido que se habían pagado parte de las cantidades adeudadas me hubiera gustado más nos hubiera gustado más que esto lo hubiéramos conocido por una respuesta

conocido esta respuesta que hoy había pasado con los turnos de oficio por una respuesta suya a una cuestión a esta cuestión pero la verdad es que al final en fin el caso es que ya tenemos

en su contestación el resto y aunque sí es cierto que algunos pocos letrados sí conocían las intenciones del departamento y otros se enteraron por la prensa a pesar de que

muchísimas reclamaciones por parte de los colegios de los abogados y varias promesas incumplidas pero en definitiva la cuestión es por qué ha habido esos retrasos consejero en el abono de los turnos ese retraso sistemático por qué

teniendo las certificaciones colegiales por qué teniendo

no se han pagado esas cantidades no se han pagado esas cantidades a los abogados abogados que ya le han avisado que han avisado al departamento que por favor se pague por dignidad

en peligro la tutela judicial efectiva que es en definitiva lo que se pone en peligro cuando no se puede garantizar la justicia el acceso a la justicia de los ciudadanos que carecen de recursos
agradezco su respuesta de ante mano gracias eskerrik asko

en su pregunta ya ha formulado la respuesta y ya ha dado cuenta de la respuesta me ahorra la necesidad de dársela efectivamente

y están esas cantidades adeudadas en disposición de las entidades financieras con las que trabajan

esta a usted le consta seguro que es así no es una cuestión nueva ni en esta comunidad autónoma ni en ninguna de las que tienen transferidas las competencias en materia de justicia de las doce

al contrario podemos decir que es un problema casi estructural casi crónico de todas las comunidades autónomas que gestionan el servicio público vinculado

y deriva en buena parte de una circunstancia del hecho de que como las liquidaciones se llevan a cabo con carácter o trimestral o semestral dependiendo de las comunidades autónomas y también de los turnos

servicios que se prestan el primer día del periodo el primer día del trimestre o el primer día del semestre nunca se pueden hacer efectivos hasta concluido el periodo el trimestre o el semestre y practicada después en la tramitación correspondiente primero

comprobación luego además en este caso se ha producido una circunstancia especial como usted bien sabe

ciento diez barra dos mil doce que alteró en euskadi el año dos mil doce el régimen de la justicia gratuita estableció con carácter general

iban a ser trimestrales excepto en un caso en el caso del turno por violencia de género

que en el año dos mil trece este gobierno haya tenido que pagar cinco trimestres con un presupuesto prorrogado que contemplaba dos semestres

al ejercicio presupuestario teniendo en cuenta que tenía un presupuesto prorrogado que contemplaba dos semestres que es lo que estaba previsto entonces esto es ha provocado una ralentización de los pagos que desemboca en la situación actual pero insisto como usted ha empezado con la buena nueva el pago ya está hecho el asunto está resuelto y le puedo asegurar que lo que a este segundo semestre

llevarán a cabo también inmediatamente una vez que se lleven a cabo las tramitaciones y comprobaciones oportunas a las que un gobierno no puede renunciar jamás eskerrik asko

gracias presidenta de nuevo muy bonito todo lo que me dice del presupuesto pero le recuerdo señor erkoreka que hay

sin disponer del presupuesto del dos mil trece en cualquier caso

es que en este parlamento se han aprobado muchas cosas una de ellas garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y la tutela judicial efectiva sin los abogados del turno de oficio es prácticamente inviable porque

no hizo nada al respecto no recurrió la ley de tasas por ejemplo no recurrió la ley de tasas

está minando la tutela judicial efectiva pero además usted se limitó a decir no queremos

ni tarta ni nada absolutamente nada de nada no hay recursos derivados de la ley de tasas para financiar la justicia gratuita pero en definitiva

están garantizando el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y esos abogados

lo hacen voluntariamente con calidad y para hacerlo tienen que pagar alquileres tienen que pagar cuotas de autónomos tienen que pagar

tienen que pagar luz agua basuras tienen que pagar

tienen que pagar cantidad de cosas seguros de rc y además tienen que vivir

es que en esta situación los únicos bastiones que garantizan el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a tener

de reclamar ante los tribunales sus derechos no pueden hacerlo

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gallastegui ya sé que no siempre es fácil cubrir el tiempo que tiene uno asignado cuando no hay nada que decir pero usted

trabajar y poner en marcha el empleo cosa que francamente ya lo sé soy consciente perfectamente soy consciente de ello lo que sí le puedo decir es una cosa en lo que a este gobierno respecta mire el segundo trimestre de este año el trimestre en el que estamos

ni en este ni en el anterior gobierno eran sistemáticos a veces sí pero sistemáticos no y no lo van a ser y en este trimestre no lo va a ser en el futuro mire

segundo tampoco va a dejar sin pagar ninguno de estos

a la justicia gratuita porque es un derecho subjetivo que está reconocido en la ley

que es lo que por ejemplo ha hecho el gobierno socialista de andalucía rebajar los módulos quitar restar

un poco antes tampoco esto lo va a hacer porque seguro que a los abogados no les va a gustar nada que el modelo socialista andaluz se les aplique a ellos y se les bajen los módulos los módulos por cierto que los de euskadi son los más altos de todo el estado español eskerrik asko